rojo solana natalia ruiz bujedo cristina

ares taboada rodolfo arieta araunabeña ibarzabal juan antonio

berriozabal bóveda jone blanco de angulo eva

carro iglesias javier casanova alonso iker

presidenta el pasado día uno de octubre presentamos una moción consecuencia de interpelación para proponer la constitución de una ponencia parlamentaria que impulsara los cambios que fueran necesarios en la ley que rige el tribunal vasco de cuentas públicas al objeto de lograr la modernización la despolitización

ningún grupo presentó enmienda el partido nacionalista vasco y el partido socialista de euskadi votaron en contra propusimos una ponencia para que los distintos grupos políticos

y porque era y es cierto que existen diferentes medidas que podrían plantearse para lograr los objetivos que pretendíamos la modernización la despolitización

votaron en contra hoy sigue siendo una obviedad lo que llevamos años denunciando

que el tribunal vasco de cuentas públicas está tomado está ocupado por los partidos políticos para la elección de sus nuevos miembros se ha vuelto a poner de manifiesto cada uno de los grupos políticos aquí presentes ha tratado de colocar a los suyos y al mayor número de suyos posible y su objetivo no ha sido ni es

y cumpla mejor sus funciones sino que los suyos los de ustedes dentro del tribunal vasco de cuentas públicas defiendan mejor sus intereses partidarios los suyos los de ustedes y esto es algo absolutamente vergonzoso que nuevamente queremos denunciar

el tribunal vasco de cuentas públicas es un caso descarado

en una institución y de politización y de falta de profesionalización

en el pasado el grupo socialista al parecer va a apoyarlo y tal cosa es sencillamente vergonzosa eh bildu y el grupo popular han criticado su elección

a los suyos además tanto un grupo como el otro han anunciado la presentación de una proposición de ley para cambiar la ley del tribunal vasco de cuentas públicas hoy

unos como otros presentan a los suyos para que formen parte del tribunal estamos por lo tanto ante un ejercicio evidente de hipocresía política no puede ser que los miembros del tribunal respondan en última instancia a los intereses de los partidos políticos de los grupos parlamentarios

este hecho impide que cumpla las funciones para las que fue creado tanto es así evidente fue en el caso epsilon hiriko que los medios de comunicación

no citaban a los distintos miembros del tribunal como consejeros del tribunal

de los correspondientes partidos políticos y en la mayoría de los casos como los propios partidos políticos insertados en ese tribunal en esta ocasión ha vuelto

la credibilidad del tribunal vasco de cuentas públicas su falta de credibilidad ya es un hecho

quedará definitivamente laminada hay que modificar por lo tanto la ley y proponer reformas y para ello hay un gran abanico de opciones

tribunal vasco de cuentas públicas u otras muchas o podemos observar qué es lo que se hace en países de nuestro entorno y desde luego hay que cambiar la forma de de estos miembros la correspondiente negociación parlamentaria se centra no tanto en el perfil técnico exigible al candidato sino en el número de miembros que corresponde proponer a cada grupo todos los grupos han mantenido este vergonzoso sistema para seguir tratando de colocar a los suyos

en la cuota que les toca nosotros sin embargo seguimos pensando que hay que cambiar radicalmente el modelo la fidelidad a una sigla e incluso la pasada trayectoria en puestos de gestión política se convierten en elementos clave la elección los tribunales de cuentas solo pueden cumplir eficazmente sus funciones si son independientes en conclusión el sistema de elección de los miembros del tribunal lo contamina todo que sus miembros sean elegidos por los grupos parlamentarios es algo absolutamente vergonzoso y que el señor bilbao salte directamente de la diputación foral de bizkaia a la presidencia del tribunal

al cielo por todo esto upyd no va a participar en la votación abandono esta farsa que ustedes han montado ahí les dejo a ustedes
con sus pactos vergonzosos y con su hipocresía política gracias eskerrik asko maneiro jauna

no tengamos la oportunidad de rebatir algunas de las cuestiones que hemos tenido oportunidad de

parlamentario poco edificante y como quien ha protagonizado ese ejercicio parlamentario poco edificante no está en esta cámara y por no copiar esas malas formas hasta aquí

en relación con este tema hay un discurso extendido en estos tiempos un discurso que

por muy bien que suene es un espacio común pero es un discurso que habla de la necesidad de prestigiar las instituciones las instituciones políticas

los órganos de control un discurso que pide

coincidimos y podríamos coincidir todos que pide garantizar su independencia

para precisamente controlar la acción de los gobiernos controlar la protección de las instituciones instituciones como el tribunal vasco de cuentas órganos de control

y que están necesitados de alejar permanentemente

alejar cualquier sombra de sospecha sobre el control de los mismos

la intencionalidad política que pudieran tener esos órganos de control esos órganos

existe un discurso extendido en estos momentos afortunadamente extendido en estos momentos pero que insisto no sería más o no será más que papel mojado si nuestros hechos no respaldan esos discursos

prestigiar nuestras instituciones y también el tribunal vasco de cuentas despolitizar aquellas instituciones aquellos órganos que están creados para controlar a los gobiernos

en la materialización y en la demostración con hechos de este discurso deberíamos de estar todos pero este debate el de hoy este punto

lamentablemente politizado porque algunos de los candidatos que se han planteado obligan a una reflexión política a compartir una reflexión política que se traduce en un debate político cuando debería de ser estrictamente técnico cuando deberíamos de estar centrándonos en exclusiva en las características técnicas

de quienes hoy se someten a consideración de este pleno por eso en primer lugar y como nosotros creemos que la política no se puede hacer a dominem sino que tenemos que hablar de contenidos

comenzar mostrando nuestro más escrupuloso y absoluto respeto político

por la figura de josé luis bilbao uno de los candidatos que plantea y que propone hoy el partido nacionalista vasco pero desde ese respeto institucional político y personal tenemos que decir que nos parece probablemente

porque es un político y un político en ejercicio y hoy se somete a la votación de esta cámara a la consideración de esta cámara la votación de una persona

un órgano de control siendo político en ejercicio siendo nada más y nada menos no solo político en ejercicio sino diputado general

algo por cierto también inédito en la historia

que se podía haber hecho de otra manera creemos que se podía haber esperado un poco más o creemos que podía haber dimitido

para ver sometido su nombre a la consideración de este pleno sin ser diputado general

porque además de la competencia técnica además de las características personales y profesionales que deben de reunir y los requisitos que deben de reunir los miembros de ese tribunal también las formas y

más probablemente que nunca también las formas son importantes

con esta propuesta y de ahí la abstención en el dictamen elevado a este pleno muchas gracias eskerrik asko sémper jauna

en esta circunstancia como recordarán en convocatoria pública a los medios explicamos con claridad que desde la oposición a un gobierno

no íbamos a obstaculizar la renovación de ninguno de los órganos dependientes de esta cámara dijimos que facilitaríamos estas renovaciones en la dirección de e i te be

y en las designaciones que se derivarían de la apuesta por el instituto de la memoria no se trataba

o gestionados desde la interinidad y no se trataba de hacer lo que nos habría gustado porque en esta cámara cada uno debe ser consciente de su realidad la nuestra es la de

de la cámara insuficiente por sí sola para impulsar los cambios y renovaciones a nuestro gusto como son insuficientes los veintisiete del pnv los veintiuno de bildu

unos lo hacemos sin complejos en unas materias con unos grupos y en otras con otras pero hay quienes en esta cámara se quieren erigir en profesores magistrales de ética política y llaman luego por la puerta de atrás para encontrar un hueco que cubra su falta de cintura

otros no se han preocupado hasta hace una semana hoy nos anuncian propuestas para cambiar la ley del tribunal vasco de cuentas

tienen razón pero donde no la tienen es en intentar arrojar sobre los demás la responsabilidad de su propia irresponsabilidad por qué no plantearon estos cambios

si ya se sabía que en estas fechas había que renovar el tribunal bien vamos a abordar esa reforma efectivamente cuando este parlamento aprobó hoy hace justo un año la ley de incompatibilidades promovida por cierto por mi grupo y que regula los conflictos de intereses estábamos haciendo un ejercicio para eliminar

o partidistas y los miembros del tribunal deben también estar afectados por esta circunstancia los socialistas hemos propuesto por nuestra parte a dos personas de acreditada experiencia

porque creemos que son óptimas para el desempeño de sus funciones a desarrollar y de eso damos cuenta los demás tendrán que responder de por qué han hecho las propuestas que han hecho no creemos por cierto que el pp se pueda presentar tampoco como ejemplo después de esas comunicaciones conocidas entre el presidente saliente

y nos llama la atención la rapidez con la que se ha movido para contar con un representante propio como si que ellos plantean fuera siempre inmaculado y lo de los demás tuviera siempre

así que lecciones pocas hay quien se ha despistado durante dos años y a última hora ha llegado dando codazos para hacerse con un asiento

es más fácil aparentar ser siempre la voz aparentemente indignada y limpia he de reconocerle al pp que ellos sí se implicaron en la renovación del ararteko

hacemos lo que dijimos públicamente que íbamos a hacer dijimos que no íbamos a aplicar las mismas políticas de bloqueo que el anterior gobierno había sufrido en la legislatura anterior tampoco en este asunto porque ni los ciudadanos ni los órganos que dependen de este parlamento

aquí estamos para hacer que las cosas funcionen bienvenidas las reformas que se plantean aunque muy tarde pero que lleguen con la humildad de quienes en todo caso

en reiteradas ocasiones nos han oído a los nacionalistas vascos a nuestro grupo parlamentario criticar los vientos y los comentarios que desde madrid se hacen considerando que son simples réplicas prescindibles

se puede ir solo y avanzar solo con el tribunal de madrid sin embargo desde el partido nacionalista vasco defendemos que la creación de este tribunal

que es necesaria la modificación o adecuación de la ley que lo regula tal vez sí pero no una reforma coyuntural y no en un escenario normativo absolutamente inestable

la aportación de josé luis bilbao al servicio público y la gestión correcta y ordenada de los recursos públicos que en todo este tiempo ha realizado resulta llamativo que algunos partidos políticos critiquen algo que ha sido históricamente habitual que personas vinculadas

pasen a formar parte del tribunal vasco de cuentas públicas y les pondré solo algún ejemplo de ello

fue miembro del gobierno vasco antes de pasar a formar parte del tribunal vasco de cuentas públicas suyo juan luis laskurain propuesto por nuestro grupo parlamentario fue diputado de hacienda antes de ser miembro del tribunal vasco de cuentas públicas milagros garcía crespo rafa iturriaga fueron miembros del gobiernos vasco

ustedes dudan de la competencia de estas personas y del trabajo que estas personas realizaron en el desempeño de sus funciones nosotros no

y todos han defendido el interés general además es importante destacar que la ley prevé que los miembros del tribunal no pueden auditar ni votar sobre asuntos

lo que viene a autorizar la incorporación de los cargos institucionales al tribunal vasco de cuentas públicas bestalde

lortutakoa las y los candidatos que les proponemos son los más idóneos señor

sin causa de incompatibilidad según se puede leer en el dictamen de la comisión de incompatibilidades de este parlamento vasco que acaba de ser aprobado

y sin causa de incompatibilidad además van a ser nombrados por la mayoría absoluta del parlamento vasco lo que les dota de la máxima legitimidad

reyes martín vicente rojo solana natalia

tellería orriols luis javier ubera aranzeta rebeka

arieta araunabeña ibarzabal juan antonio arraiz barbadillo hasier

garcía ruiz jaunak cuarenta y tres quintanilla

garcía ruiz jauna quintanilla angulo jauna crespo del campo andrea bilbao eguren jauna melero

sí gracias señora presidenta efectivamente estamos ante
una ley para la prevención y corrección de contaminación isiltasuna mesedez del suelo proyecto que

a la que ya eudel en su momento informó desfavorable la complejidad de aplicación de esa ley el departamento tuvo que remitir unos criterios interpretativos para su aplicación con los que los ayuntamientos

que contenía esta ley que se podrían calificar de muy complejos prolongados en el tiempo por la demora de pronunciamiento del órgano ambiental

la ley que hoy hemos aprobado no tiene grandes modificaciones respecto a la normativa anterior

de la regulación anterior y la incorporación de los criterios interpretativos del órgano ambiental el resto de comunidades autónomas las limítrofes nos afectan de manera importante aplican la ley

un marco legal mínimo que dista mucho de nuestra exigente normativa no solo de la gestión que deben realizar los ayuntamientos sino especialmente de las obligaciones de los propietarios y promotores de actividades industriales

desfavorable para los territorios de la comunidad autónoma del país vasco entendemos desde el grupo popular que este proyecto de ley se debería haber tramitado después de que esta cámara aprobase la modificación de la ley

quien determine el régimen jurídico de las diferentes tipologías de actividades dejando de este modo a los ayuntamientos sin poder integrar en sus

las enmiendas que desde el grupo popular hemos presentado algunas de ellas importantes han ido encaminadas a ampliar los supuestos de exención de los procedimientos de declaración en materia de calidad del suelo dado la evolución que el sector industrial ha tenido

y orientada a actividades en pequeños pabellones y encaminadas a otros usos el uso de equipamiento el cultural los espectáculos universitarios administración el uso terciario

y el uso productivo otras de nuestras enmiendas han ido encaminadas a elevar las cuantías de las infracciones en todos sus tramos que también han sido aceptadas

contamina paga teníamos otro grupo de enmiendas que estaban encaminadas a la mejora legislativa en la parte técnica no hemos tenido tanto éxito en esas enmiendas pero aún así no hemos considerado motivo suficiente para no apoyar el texto que esta mañana se ha puesto a

que es una ley que podía haber sido mejorada pero que bueno ha quedado en unos mínimos aceptables pero que habrá que trabajar en propiciar que sea mucho más ágil la gestión de los ayuntamientos y que sea más acorde con el entorno

de los ayuntamientos que nos rodean de otras comunidades autónomas nada más muchas gracias eskerrik asko lópez de ocariz anderea

a esta modificación de ley porque la entendíamos necesaria además de demandada

la elaboración del nuevo anteproyecto de ley era una necesidad que surge de la experiencia de años de aplicación de la vigente ley uno barra dos mil cinco sin perder de vista que las primeras actuaciones de saneamiento se

este anteproyecto de ley de prevención y corrección de la contaminación del suelo supone un esfuerzo grande tanto para lo público como para lo privado en lo que tiene que ver con la mejora de la propia ley el ámbito de la prevención adquiere su valor como acto y esfuerzo administrativo donde el resultado

entendemos también que hay que seguir profundizando en ello incorporando los criterios en otros ámbitos normativos compartimos el criterio de trasladar a normas

de la ejecución de la ley este anteproyecto de ley tiene un carácter muy técnico que no solo es de uso de los expertos si no de profesionales y particulares que no lo son y que sin embargo se ven afectados por el mismo ha sido importante por tanto que se clarifiquen al máximo los textos como es el caso de las definiciones también ha sido importante crear exenciones al procedimiento ordinario

entendemos el criterio de trasladar ciertas tramitaciones de menor riesgo ambiental a comunicación no solo agiliza la disponibilidad de los permisos a los promotores

una mayor relevancia lo que a su vez permite a la administración aplicar un mayor

y fiabilidad con tales profesionales un aspecto a considerar

sino los datos económicos y de empleo asociados a las mismas y los volúmenes de materiales escavados

sino también el efecto positivo generado en el entorno bien en términos de

bien en mejoras en los ecosistemas los ciudadanos deben saber que el importante conste que están soportando tiene unos efectos positivos medibles

sin que se justifiquen mejoras en los ámbitos señalados no puede quedar la idea de que el suelo se trata por tratar en lo referente a la protección de las aguas que el agua tiene

importante lugar en esta modificación de ley nuestra situación no es tan crítica como en otros estados europeos porque el agua subterránea no es tan importante a día de hoy en abastecimiento riego

es un recurso estratégico y debería de haber un mayor esfuerzo en el control y seguimiento de la calidad de esas aguas

por ello parece que hay que dar más relevancia a este aspecto en los diferentes documentos que se emitan detalles que de acuerdo con el nuevo texto deberán y deben pasar a formar parte

entendemos que esta ley ha sido reclamada aunque a veces no entendida por muchos sectores de la sociedad los que los tienen afectados entendemos con el acuerdo unánime que hemos llegado en la modificación de esta ley va a mejorar la tramitación y la aplicación de la misma y por tanto entendemos que la puesta en marcha de esta ley facilitará lo que hasta ahora había sido demandado

quedaba desde nuestro punto de vista corta quedaba coja y además quedaba subordinada al derecho civil

proponíamos con la primera de las enmiendas suprimir la mención de la exposición de motivos que determina el techo que debe tener nuestra iniciativa legislativa textualmente

límites delimitados demasiada delimitación para nosotros y nosotras demasiado corsé un techo demasiado bajo que además depende de nosotros que no está en nuestras manos esta ley parece más preocupada por los límites que por la extensión que deba adoptar extensión que a la vista a donde han llegado otras comunidades autónomas todavía estamos a años luz de encontrarnos con semejante limitación nace pues

amputada la segunda de las enmiendas que reservábamos pretendía recordar que el artículo uno dedicado a las fuentes del derecho además de otras leyes nuevamente

existen otras leyes vascas de contenido civil y que además debían de constar como fuente precisamente introducíamos en la enmienda un listado de las leyes de tal contenido

acerbo en un conjunto que deberemos de llamar derecho civil vasco por último introducíamos una enmienda de modificación del artículo veintidós

dedicado a las formas de testar un ejemplo de la subsidiaridad de esta ley de sus continuas remisiones al código civil

acepta adopta como código de referencia entendíamos que se debía de enumerar todas las formas de testar posibles en este territorio y es por eso que simplemente indicábamos cuáles serían los métodos de testar según esta ley

según esta ley nuestra voluntad es precisamente avanzar en nuestro sistema de derecho civil rompiendo amarras con ese derecho civil común estas

posición política estas enmiendas no venían a reflejar sino que esta ley adolecía de ambición que se presenta como una ley inferior subordinada sometida

y esas enmiendas vienen a reflejar de manera evidente la voluntad de eh bildu de dar los pasos necesarios para superar esta situación y enfrentarnos a este debate

el dedo en la llaga sino única y exclusivamente mirar más hacia adelante horregatik

si deben de tener una vocación de permanencia esta no esperemos que esta ley nazca con la vocación

e inmediatamente desarrollada si se prefiere desbordada en sus estrechos límites en su fragmentación territorial en su reducido

no queremos que se entienda nuestra abstención a la propuesta de ley de hoy como un rechazo al trabajo realizado como un desprecio a los esfuerzos hechos

a una nueva fase que debemos acometer consideramos con premura y determinación una tarea en la que no puede faltar nadie ni técnicos ni académicos ni operadores del derecho ni representantes territoriales ni legisladores nuestra abstención

a seguir trabajando para incluir y dar coherencia a leyes ya existentes o que pronto existirán y que tienen contenido de derecho civil vasco

abstención reflejará un llamamiento a constituir instituciones de derecho civil actuales y que sirvan además para toda la ciudadanía nuestra abstención

el reto ambicioso de profundizar y desarrollar el derecho civil vasco para vertebrar país eskerrik asko eskerrik asko arzuaga jauna

muchas gracias señora presidenta la verdad es que no pensaba intervenir en el turno en contra pero a la vista de algunas manifestaciones

que debería corregir algunas cosas se nos dice que esta ley está subordinada al derecho común

desde hace más de quinientos seiscientos o setecientos años y casualmente esta ley lo que hace es que en esos territorios operen instrumentos y derechos que ese derecho común que usted dice

por lo tanto no veo dónde encuentra usted la subordinación a un derecho común

y lo que la gente conoce porque estamos hablando de derecho civil esto de hacer país con el derecho civil oiga el derecho civil no sé si usted lo sabe pero esta ley también lo recoge parte del principio de la libertad

los que mejor entienda que necesita para digamos realizar su vida

y esta ley lo que hace es dar más opciones a algunos que antes tenían menos precisamente en esos sitios donde usted dice

ya le digo completo y desde luego en gipuzkoa salvo la excepción de la trasmisión del caserío que hicimos en este parlamento hace no tanto tiempo al cien por ciento regía al cien por ciento por lo tanto me parece que venir a decir eso aquí con esta ley que hace precisamente lo contrario pues no lo entiendo hombre que la ley nace según usted para cambiarla pasado mañana pues ya me gustaría saber exactamente qué quiere usted cambiar de esta ley yo le voy a decir que esta ley se lleva trabajando en ella desde hace más de diez años por mucha gente para resolver problemas

en el día a día y resuelve los problemas de la vecindad vasca se crea la vecindad civil vasca

con otros regímenes forales se mantiene la

las peculiaridades forales de cada territorio oiga se crea una vecindad vasca que otorga mecanismos a gente que antes no lo tenía si los quiere usar porque estamos hablando de libertad

tenemos más fórmulas en este país hace mucho más tiempo además de la testada y la intestada tenemos el testamento por comisario

pero desde luego digamos que sería de otro tipo y en esta ley

se permite cosas que hasta ahora no se podían hacer como es favorecer o a la pareja de hecho que se queda viuda tener más mecanismos de protección mientras que en esos sitios donde usted decía

hoy no hoy prácticamente tiene el usufructo poderoso en todo el país vasco el que lo quiera usar el testamento por comisario en todo el país vasco el que lo quiera usar

y se regulan defecto de pacto en los regímenes matrimoniales

el común que es el que está el que existe y el que la gente conoce básicamente en gipuzkoa y

y el de separación de bienes para las parejas de hecho en defecto de pacto

de la gente porque la gente tiene la libertad y la posibilidad de fijar el régimen que estime más conveniente

si tiene mucho que ver con el código civil que aquí

a todos ellos a la hora de fijar la herencia y los herederos se establece

hasta donde yo recuerdo el código civil establece dos tercios de legítima y en el tercio que resta pues podrá regir heredero el que quiera y cómo quiera

y por lo tanto yo si

pero los argumentos permítame que le diga que no he entendido absolutamente ninguno porque lo que hace esta ley es todo lo contrario de lo que usted ha dicho que es esta ley y le recuerdo que aquí no estamos

ni para hacer país ni para hacer patria estamos para resolver problemas de la gente

y no para que algunos pretendan pasar a la historia haciendo no sé qué megaleyes o no sé qué cosas que nadie pide en la calle para nada

agradeciendo a toda la gente que ha trabajado durante todos estos años para que este proyecto de ley pueda estar aquí y si me permiten pues lo reflejo en la persona de adrián celaya que

bai eskerrik asko oso labur tal vez la muestra más fehaciente

el que sea el pp el que nos recrimine esta actitud tal vez la satisfacción que usted muestra señor damborenea por esta ley es la mejor justificación

como decía que se queda corta que se queda coja que se queda superficial que mantiene instituciones tal vez con

histórico algo que usted continuamente pone en valor pero que consideramos que

mantiene eso que usted ha llamado además peculiaridades que para nosotros no son

cuestiones muchas veces con apego a la antigüedad digamos pero no a las necesidades a las urgencias

a los académicos no voy a entrar a hacer una discusión sobre el contenido

en cataluña será eso lo que habrá que trabajar y será esa la que habrá que difundir y

precisamente a todos los territorios a todos los ciudadanos de todos los territorios

de que estamos haciendo un derecho civil que vertebre país usted dice que siempre ha sido el código civil que se utilice como

como derecho digamos del que emanan estos otros derechos forales así ha sido en los últimos quinientos o seiscientos años y yo lo que le digo es que

de espaldas a instituciones representativas de estos territorios

a instituciones académicas votamos abstención por el texto pero votamos abstención también por el contexto por nuestra posición política

o si lo desean de otra manera no vamos a dar nuestra adhesión si no es la crítica besterik ez eskerrik asko eskerrik asko arzuaga jauna

sí muy brevemente señora presidenta porque yo no recuerdo haber dicho en ningún momento que los derechos forales

digo para que quede claro lo que he dicho es que en gipuzkoa y en álava ha regido el código civil desde hace muchos siglos

lo cual no quiere decir que el fuero de bizkaia venga del código civil ni nada parecido lo digo para que quede claro que yo no he dicho eso

buenos días señorías bien voy a empezar diciendo una cosa que va de suyo el derecho es una ciencia social que se inspira en postulados de justicia y que constituye el orden normativo e institucional que regula la conducta humana en sociedad dicho de otra forma

los conflictos en el seno de las sociedades y el derecho civil

vestimos a las realidades de las personas en el ámbito privado y señorías las realidades de las personas sus relaciones privadas no son inmutables cambian se modifican con el tiempo y las instituciones jurídicas también deben hacerlo

facilitar la vida de las personas y digo la vida de las personas

de actos que producen efectos jurídicos todos los días

matrimonios se establecen o se disuelven regímenes

se realizan infinidad de negocios jurídicos el pasado veintitrés de abril con la toma en consideración de esta proposición de ley que hoy culminamos

reclamada con insistencia por los operadores jurídicos abogados notarios y registradores reclamaban del legislador

pusiera equidad e igualdad en el puzzle normativo en la medida de lo posible y garantizara seguridad en el tráfico jurídico que en definitiva señorías ajustara las costuras del traje al cuerpo que permitiera comodidad

porque esta ley señorías como también ha dicho el señor

así literalmente en la ley afecta al derecho de los ciudadanos a organizar su vida su familia y su patrimonio y recoge por primera vez

una institución clara y sobre todo útil la vecindad civil vasca que es en definitiva la que va a determinar la ley aplicable y esperemos atienda debidamente la resolución del conflicto de leyes las leyes que hoy derogamos constituyó

desde el punto de vista de la normatividad porque una parte muy importante de las fuentes del derecho privado en nuestro país provienen del derecho constitudinario de la costumbre

histórico diferente con una realidad distinta y que

es de lo que se trata de los ciudadanos del siglo veintiuno

se convirtiera en realidad pero que el amplio acuerdo en el origen así como haber contado con todos aquellos que aportaron su visión academia vasca del derecho la universidad colegios de abogados una especial mención

y también haber contado con quienes tendrán que aplicar esta nueva normativa abogados notarios registradores

que la aprobación definitiva no iba a demorarse demasiado y así ha sido hoy dos meses después aprobamos esta ley que nace para poner al día nuestra

las carencias del derecho privado vasco garantizando certezas igualdad y seguridad jurídica

así que termino por donde empezaba con esta proposición con esta ley que hemos aprobado recuperamos un concepto que los socialistas valoramos en especial

el proceso de construcción de la euskadi del siglo veintiuno ampliando el catálogo de derechos de la ciudadanía vasca aprobamos normas señorías

ni a las tradiciones y con un acuerdo amplio

de elección porque elegir y decidir es sinónimo de libertad efectivamente y lo decía montesquieu

es el derecho de hacer lo que las leyes me permiten gracias eskerrik asko gallastegui

alde horietatik oso oso inportantea esta ley surge tanto por las cuestiones que se han suscitado

como por la necesaria adaptación a las nuevas realidades legislativas por citar algunas ahí tenemos las parejas de hecho la custodia compartida la mediación

asimismo es preciso citar el derecho europeo y su posible adaptación al derecho civil vasco esta ley recoge el acuerdo adoptado por este parlamento con fecha veintiocho

voy a mencionar brevemente alguno de los contenidos de la ley cuestión de importancia capital que cabe resaltar es la transición de un derecho civil propio de cada uno de los territorios históricos a un derecho civil vasco también se establecen los principios del derecho patrimonial

y se recoge una serie de instituciones clásicas y conocidas del derecho civil foral vasco así

por lo tanto algunas de las referencias que se han hecho antes al código civil creo que se han hecho de una manera errónea

que es competente la comunidad autónoma del país vasco para el establecimiento de las normas de conflicto interno

y las vecindades civiles locales de la comunidad autónoma vasca por eso las referencias que se han hecho antes respecto al código civil creo que han sido incorrectamente interpretadas aunque como no es un turno de réplica

que aunque muy someramente nos muestran la gran importancia de la ley que hoy hemos aprobado estamos hablando nada menos que de la columna vertebral de las normas que regulan las relaciones privadas en nuestra sociedad para terminar

desde la publicación de la ley tres barra noventa y dos han presentado una serie de iniciativas que han permitido proseguir con el avance y la actualización del derecho civil foral vasco

por la iniciativa de diferentes ámbitos de la sociedad vasca en realidad estamos ante una ley de iniciativa social sin recogida de firmas pero aportando los contenidos de la misma eskerrik asko bihotzez denoi

gracias presidenta presentar unas bases mínimas de un acuerdo unánime del parlamento es para mí un honor

haber tenido la oportunidad de elaborar este informe he de confesar que personalmente como inspectora de trabajo que durante veinte años

habilitar el camino de la reparación es un alivio y una compensación de mi labor política insuficiente pero importante en la actualidad ya es claramente admitido que existe una fuerte evidencia en la relación entre los casos de mesotilomas y el consumo de amianto en los distintos países hace quince años

pero todavía quedan pasos muy importantes que dar y en esta línea hoy vamos a dar un paso de gigante y aprobaremos este dictamen de forma unánime porque

en la necesidad de su creación todos los grupos parlamentarios de esta cámara estamos de acuerdo en este dictamen el parlamento vasco ha decidido afrontar uno de los temas más graves a los que se enfrentan

que han estado expuestos al amianto y por ello consideran necesario la creación de un fondo de compensación que sirva para resarcir a los afectados en parte el daño sufrido por la exposición al amianto en el pasado todos los comparecientes han manifestado

y además fundamental en los casos en las que las víctimas han trabajado en distintas empresas o las empresas en las que se produjo la exposición ya no existen

muchas empresas fundamentalmente pequeñas dado que esas indemnizaciones son difíciles de encajar en las mismas nadie más lo ha hecho antes la vía la abrimos en euskadi

y hemos llegado en esta a mínimos compartidos pero el camino hay que seguir transitándolo

y reuniones realizadas en la novena y la décima legislatura que junto con las aportaciones de los responsables políticos

ha facilitado que la ponencia haya formulado sus consideraciones y veintiuno conclusiones en esta presentación me limitaré a hacer referencia a las más importantes

la constitución de la ponencia ha sido oportuna y beneficiosa teniendo en cuenta el volumen de afectados por exposición a fibras de amianto existente

hasta el dos mil veintitrés a partir de esta fecha se estabilizarán las cifras y se iniciará una rápida tendencia

esas son las previsiones sin embargo y a pesar de ello todavía en españa

ningún fondo de compensación para los mismos como ocurre en otros países de la unión europea en la ponencia se ha valorado como necesario abordar la conveniencia de crear este fondo de compensación para los afectados por amianto y su ámbito de aplicación si estatal o de comunidad autónoma así como su forma de financiación y creemos

que sea el estatal no por eludir responsabilidades sino por dar garantías a los afectados un fondo en euskadi no garantiza suficientemente a los afectados

reconozca una enfermedad profesional derivada de un material cuya utilización fue aceptada en el pasado y que ahora se ha convertido

una dificultad para la compensación de sus patologías dado el periodo de latencia para que se manifieste la enfermedad desde el momento de la exposición porque es muy prolongado en patologías más severas entre veinte y treinta años en asbestosis y cáncer de pulmón y entre cuarenta y cincuenta años en el mesotelioma pulmonar ello genera

cuando se manifiesta la enfermedad los trabajadores ya están jubilados o las empresas han desaparecido dado que podemos estar refiriéndonos a exposiciones que se produjeron entre veinte ó cincuenta años antes o los trabajadores han podido prestar servicios en diferentes empresas

esto genera una dificultad de identificación de las empresas responsables del pago de indemnizaciones

a los afectados muchas de esas empresas han podido sufrir además con el paso del tiempo reconversiones escisiones y transformaciones que además pueden dificultar mucho más la identificación de cual puede ser el actual responsable ello conlleva por parte de los afectados

enorme y un dificultoso esfuerzo para identificar a la empresa a la que tienen que reclamar quedando estos afectados en muchos casos sin compensación a pesar del daño sufrido en su salud o haber fallecido

las víctimas han de luchar para reclamar sus derechos con los organismos de la seguridad social las mutuas y en los tribunales los trabajadores afectados y sus familiares

procesos judiciales de un elevado coste económico porque el problema es que no vale con tener la enfermedad sino que hay que demostrar que se ha trabajado expuesto al amianto y muchas de las empresas no facilitan la documentación y las pruebas para ello los afectados encuentran la dificultad de demostrar la exposición y en qué empresa o empresas se produjo esta

de lo que resulte del proceso y su prolongación en el tiempo ya que se trata de procesos muy largos y además para los afectados

y perjuicios un año desde el fallecimiento de la persona o del reconocimiento de la enfermedad profesional muchas veces la afección

que cuando quieren reaccionar se ha expirado el plazo para poder reclamar sus derechos todas estas dificultades justifican la petición de un fondo de compensación el fondo de compensación consigue que aquellas familias o trabajadores afectados que tienen vedada la vía judicial

vean compensado el daño aunque sea en parte con las cuantías que se determine que deban percibir pero para poder contar con el fondo de compensación es necesario también contar con una financiación que la nutra como financiarlo

lo que implicaría que necesariamente tiene que tener un ámbito estatal o por cotizaciones solidarias de los empresarios estos días hemos leído la sentencia que reconocía los derechos de una mujer por lavar la roja de trabajo de su marido que contendría amianto

no expuestas laboralmente sino afectadas por contaminación ambiental o doméstica para estos supuestos el sistema de compensación actual es inoperante

es realmente elevado los datos constan en el informe y seguirán aumentando

por ello tiene gran importancia plantear la necesidad de la existencia de un fondo de compensación ya dentro de la unión europea existen tres fondos de compensación para afectados por exposición a fibras de amianto en francia el fiva en bélgica el afa y en holanda el ias

a la normativa de la seguridad social de cada país solo contamos con tres ejemplos fiables a partir de aquí habrá que valorar si llegamos al supuesto francés

o nos quedamos con un sistema de cobertura inferior es evidente que el ejemplo francés es el más completo y puede ser comparable porque se produce

lo que se ha producido o ha pasado en francia nos va a pasar a nosotros están claramente recogidos en el dictamen las diferencias de los tres modelos y por ello no voy a entrar en ellas

osalan manifestó en sus comparecencias que a la hora de plantear la creación de este fondo de compensación hay que valorar tres parámetros el número de población activa existente la cantidad de amianto consumida y el número de fallecidos directamente afectados en españa entre mil novecientos sesenta y mil novecientos noventa y cinco se han consumido

un treinta por ciento menos que la cantidad consumida en francia lo que nos permite extrapolar

dependiendo del sistema de compensación que fuera elegido además hay que tener en cuenta que dado el periodo de latencia la gran mayoría de los casos se diagnosticarán cuando ya no haya una relación laboral por lo que a los afectados

solo tendrán la posibilidad de dirigirse directamente a la seguridad social por ello

es que las indemnizaciones y las pensiones salgan de las cotizaciones de la seguridad social a nivel estatal tras ser reconocida la enfermedad profesional y se propone que ese fondo de

sea a nivel estatal y no de comunidad autónoma una de las razones que se argumentan para defender este carácter estatal del fondo es que el uso del producto fue autorizado por el estado hasta el dos mil uno y reconocido como enfermedad profesional por la seguridad social por lo que

responsabilidad deberá asumir el sistema de las consecuencias derivadas de esta situación además es

sino tiene ámbito estatal se pueden generar desigualdades según comunidades autónomas la creación del fondo es importante porque es la oportunidad de resarcir daños a las personas afectadas sin que tengan que pasar por todos los juzgados

o están fallecidos y son sus familiares los que tienen que reclamar los fondos la creación de este fondo propiciaría una indemnización a las víctimas afectara a intereses de las empresas o la desaparición de algunas de ellas por no poder asumir el coste de las indemnizaciones exigidas por los afectados

por la situación económica pero seguramente gestionando mejor y organizando mejor los fondos de cotizaciones de los empresarios

que gestionan este dinero se podría conseguir dinero suficiente para financiar el fondo de compensación pero además el fondo ha de ser eficaz en la rapidez de su respuesta y ha de ser un fondo cuyas prestaciones

judicial auspiciado por el estado y la seguridad social para que desanime a los afectados de acudir a la vía judicial y además con indemnizaciones

en los que se ha creado el fondo se han reducido las reclamaciones judiciales el fondo se crea para superar una injusticia para que todas las víctimas se les compensen por igual salvo que una víctima asuma el riesgo de acudir por su cuenta a la vía judicial también se recoge en la conclusión quince

el estado las comunidades autónomas la seguridad social

empresas y trabajadores y los afectados el fondo de compensación

dentro de su ámbito de cobertura además de los trabajadores expuestos la exposición ambiental y doméstica contamos con ejemplos a seguir es costoso

de este grave problema de una manera más digna y acorde a un país europeo habrá que considerar sin embargo cuál de los modelos europeos expuestos

a seguir en nuestro país su creación puede ser costosa pero se conseguiría la resolución de demandas de los afectados de una forma ordenada la eliminación

elevada de conflictos y reclamaciones judiciales agilizar el sistema y ahorro de tiempo y dinero y un calvario para los afectados por ello proponemos al congreso de los diputados la creación de este fondo pudiéndose crear un grupo de trabajo que decida todas las cuestiones recogidas en las veintiuno conclusiones de forma consensuada y que figuran en el dictamen

la conveniencia de elaborar una ley para la creación y financiación de un fondo de compensación para afectados por amianto merece la pena
y es de justicia para las víctimas nada más muchas gracias eskerrik asko